dugun ideiaren inguruan por lo que se refiere al medioambiente

y al que estamos sometiendo a un gran desequilibrio que hay que corregir el cambio climático

el calentamiento global ha sido causado en gran medida por las naciones industrializadas y euskadi es una de ellas no obstante para la resolución del problema del cambio climático se requiere una acción concertada a escala mundial por ello este otoño se celebrará en parís una conferencia en la que se sentarán las bases para garantizar el control

euskadi forma parte de la alianza de regiones y estados asociados para la reducción de las emisiones de carbono

la convención marco de las naciones unidas para el cambio climático fue adoptada durante la cumbre de la tierra de río de janeiro en el noventa y dos entró en vigor el veintiuno de marzo del noventa y cuatro y ha sido ratificada por ciento noventa y seis estados conocidos como las partes francia va acoger y presidir efectivamente la vigésimo primera conferencia de las partes en parís del treinta de noviembre al once de diciembre del dos mil quince

que debe desembocar en un nuevo acuerdo internacional sobre el clima aplicable a todos los países con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados centígrados como dice ban ki moon no hay plan b porque no tenemos un planeta b cada país en parís lo que piensa hacer lo que debe hacer para luchar contra el cambio climático pero previamente deben hacer todas sus contribuciones a esta cumbre

hemos entrado en una dinámica positiva de aplicaciones de acciones concretas intercambios de buenas prácticas y transferencias de conocimientos que demuestran lo que las personas consiguen hacer y que incitan a la movilización de todos el éxito de parís

opinan la mayor parte de las partes implicadas se apoyará sobre cuatro pilares la consecución de un acuerdo universal bajo la convención que entre en vigor en dos mil veinte las contribuciones nacionales con objetivos de la convención el aumento al apoyo financiero para la acción en países

y aumentar la cooperación para la acción con la participación de los gobiernos no solamente estatales sino de todos los niveles euskadi ha sido siempre un agente activo en foros internacionales haciendo oír la voz de los gobiernos subestatales

a lo largo de este año dos mil quince euskadi está siendo también asimismo proactivo a través de las redes de las que formamos parte esto es climate group energy encore iclei en el caso de

creada con la declaración de monreal de dos mil cinco donde ejercemos el papel de liderazgo para europa

américa del premier of quebec y siendo para asia

donde se ha adoptado la declaración de seul construyendo un mundo con acciones locales

participaremos también en julio en lión en la cumbre clima y territorio donde gobiernos no estatales compartiremos nuestras contribuciones en el camino a parís guzti honekin

el gobierno va a seguir haciendo un esfuerzo por la cohesión social y también por el apoyo a la empresa porque sabemos que el empleo lo crea la empresa no se crea por decreto ni lo crea el gobierno ni las diputaciones ni los ayuntamientos

sabemos que el crecimiento es fruto de un esfuerzo colectivo

colectivo y que la situación a mejor es gracias también a ese esfuerzo colectivo

también del empleo y la reducción de la tasa de paro hasta el trece coma siete por ciento el crecimiento económico

nuestra prioridad es convertir ahora ese crecimiento en creación de empleo son dos vectores reactivación económica y generación de empleo soy realista

aumenta la exportación crece el consumo las empresas invierten y empiezan a crear empleo y el esfuerzo del gobierno es apostar por nuevos sectores que nos permitan mantener

ser realista es ayudar a las empresas y a la economía para que se cree empleo

basada en la industria y en servicios de alto valor que garanticen el futuro del país

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on lehendakari los socialistas creemos que solo un empleo digno un salario digno
ciudadanos libres para tener una vida digna y nos lo han oído muchas veces y nos lo escucharon también en el último pleno en noviembre relativo al empleo y a la pobreza

la realización de un estudio específico con respecto a la pobreza laboral

específicas y efectivas para corregir esa situación nosotros los socialistas lo considerábamos muy urgente por eso en nuestra propuesta de resolución iba con un plazo de tres meses el grupo que soporta al gobierno nos solicitó una ampliación de plazo a seis meses el plazo está

en relación con este estudio porque hasta ahora la única novedad que hemos encontrado o que hemos escuchado por parte de su gobierno señor lehendakari es

nota que hay signos económicos positivos pero la verdad es que si nos atenemos a los informes del eustat a las encuestas del eustat vemos que hay

que no encuentran razones para sonreír porque según esos datos

el número de adultos que viven en hogares donde ninguno de sus miembros trabaja y en el caso de las mujeres

la población sobreocupada trabaja más de cuarenta y cinco horas semanales con menos salario a pesar de tener unas tasas altas de desempleo la población

trabaja menos de quince horas semanales y eso se ha triplicado y no podemos dejar que incluso ahora mismo como usted mismo decía que las perspectivas globales son mucho mejores que el gobierno permanezca inactivo y no aproveche estas circunstancias globales

y además romper la brecha de desigualdad que se está instalando entre nosotros por eso en ese pleno monográfico de noviembre compartíamos con toda la cámara la necesidad de elaborar este informe por eso le preguntamos hoy cuáles son las actuaciones específicas que su gobierno

la pobreza laboral en euskadi eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora mendia usted conoce las

el acuerdo para impulsar la economía productiva y la creación de empleo firmado con su partido las partidas incorporadas a los presupuestos dos mil catorce y dos mil quince

el programa marco para el empleo y la reactivación económica aprobado y evaluado con su partido el nuevo sistema tributario y el plan de lucha contra el fraude

usted conoce el plan de empleo aprobado en enero de dos mil catorce y que cuenta con doscientos cincuenta y ocho millónes de euros este año ha comenzado ya a dar sus frutos

y en relación al anterior el último trimestre del año pasado no ofrecerá

los resultados deseados por el efecto estacional de la navidad pero en relación a hace un año mostrará que hay

la tasa de paro ha bajado del quince coma cinco por ciento al catorce coma ocho por ciento la tendencia es positiva señora mendia en términos interanuales aumenta la ocupación en euskadi

se reduce en paralelo la evolución favorable es común en los tres territorios reconocemos las dificultades de creación de empleo pese al crecimiento especialmente las dificultades de un empleo de calidad por ello

la tendencia de salida de la crisis se confirma no estamos en recesión sino en crecimiento por primera vez desde el inicio de la crisis se genera empleo poco a poco pero no despreciemos cada poco

el crecimiento trae empleo el crecimiento sostenido trae su consolidación en empleo de calidad y pienso personalmente además como lehendakari que hemos de insistir

en el empleo juvenil en el esfuerzo también por contratos estables eskerrik asko

lehendakari conozco perfectamente el esfuerzo que los socialistas vascos hemos hecho en esta legislatura

por continuar con las políticas que iniciamos en el gobierno socialista y que sentaban las bases no solo de la modernidad de este país sino también la oportunidad de que euskadi ganara el futuro cuando saliesemos de la crisis ahora que gracias al concierto internacional que no al esfuerzo de los gobiernos porque que el barril de brent esté más barato

ni de mariano rajoy ni de usted señor lehendakari estamos en mejores condiciones para salir de la crisis pero realmente para eso se necesitan políticas ambiciosas políticas ambiciosas y yo sé lo que ha hecho mi grupo de esfuerzo pero desconocemos exactamente más allá

del acuerdo presupuestario qué políticas ambiciosas están haciendo ustedes porque por ejemplo en una política que nosotros consideramos clave que es la innovación lo que sí sabemos es que cuando nosotros estábamos en el gobierno que era un momento muy malo de crisis con un momento malísimo de ingresos económicos supimos apostar por la innovación y estuvimos en la media europea ahora que gracias a nuestro esfuerzo tenemos una mejor fiscalidad los gobiernos gozan de mayor recaudación y puede haber una mayor apuesta por la innovación

europea eso es lo que encontramos por lo tanto nosotros lo que le insistimos señor lehendakari es que apruebe que aproveche estas circunstancias económicas favorables para

a la innovación a la inversión en innovación yo no sé cómo le molesta a usted

y usted tiene que primar en sus discursos el esfuerzo del partido socialista si es un esfuerzo compartido reconozca que en ese esfuerzo compartido estamos otros

mire usted habla de creciente pobreza pero el estudio de atlas de la crisis del centro superior de investigaciones científicas español acaba de certificar la solidez económica y social de euskadi

ocho de las diez localidades menos afectadas por la crisis son vascas es fruto de un esfuerzo colectivo al que me refiero permanentemente también con otros grupos de la cámara

especialmente ahora que salimos de la crisis y que el entorno efectivamente es más favorable pero el entorno también lo ayudamos a que sea mas favorable todos los que hacemos partícipe de ese esfuerzo compartido nuestra propuesta es seguir garantizando la cohesión social los servicios esenciales de salud educación y protección a las

cuestión prioritaria manteniendo el modelo vasco de protección social y también el apoyo a la empresa a la economía real en todos los sectores yo he pedido al mundo de la empresa su compromiso por la creación de empleo confianza en el futuro económico que ya han reflejado esta misma semana los propios empresarios he pedido implicación en generar inversión y empleo tras el esfuerzo que han realizado en renovar equipos

en mantener el empleo esfuerzo que reconocemos lo hago hoy también en el parlamento el esfuerzo compartido eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

gracias señora presidenta muy buenos días lehendakari encaramos ahora ya

ya dos tercios de la misma una legislatura que como se ha dicho aquí

intervenciones ha sido difícil complicada por la crisis económica pero también tengo que decirle que la sensación que tenemos

esperábamos mucho mas para modernizar este país y para relanzarlo gracias precisamente y como se ha reconocido aquí a nuestra mejor posición de entrada en la crisis económica

dibujó una sonrisa diciendo que tiene la convicción de que estamos en la buena dirección económica social y política

lehendakari me alegro de que sea así es más usted avanzó que la industria experimentaría un crecimiento sostenido del uno coma ocho por ciento para el conjunto del ejercicio pero que llegará a alcanzar el dos coma dos en el último trimestre

marcará un perfil de crecimiento sostenible apenas unos días después conocimos los datos reales lehendakari

no solo no crece si no que el pasado mes de febrero fue un uno coma ocho menor que el mismo mes del año anterior

es la clave del crecimiento en euskadi van a presentar una nueva previsión para el sector de la industria vasca

que esta llegará a alcanzar un crecimiento como el que expresó muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

actitud de cautela en las previsiones de crecimiento porque

costará tiempo y esfuerzo salir de la crisis ya me gustaría a mí volver a los datos anteriores al año dos mil siete de la noche a la mañana de un día para otro

se realizan sobre tendencias y sobre datos estructurales por ello el gobierno vasco mantiene sus previsiones de crecimiento del dos coma tres por ciento para la economía general y del uno coma ocho por ciento parala industria mantenemos esta previsión

un uno por ciento los informes económicos de las instituciones financieras de todas ellas

son incluso más positivas que las del propio gobierno vasco estos informes constatan que la empresa vasca está recurriendo al crédito para financiar inversiones y esto significa confianza y crecimiento usted hace referencia a los bienes de equipo en su pregunta y dice que repuntó solo un cero coma ocho por ciento

que había retrocedido el siete coma dos por ciento

siete coma dos por ciento en este epígrafe se integra la actividad de maquinaria y equipo con mucho peso

y ha crecido el dos coma tres por ciento se integra también el material de transporte ferroviario con una caída del ocho coma nueve por ciento ahora bien

o de talgo avalan las previsiones de crecimiento además el gobierno mantiene sus programas renove máquina herramienta así como las ayudas

hoy mismo en los medios de comunicación se recoge que los pedidos de la máquina herramienta vasca

un treinta y nueve por ciento en este primer trimestre gracias a la recuperación de la economía española en su conjunto y el impulso también

estamos intentando abrir también incluso con mi propia presencia en estados unidos por lo tanto mantenemos nuestras previsiones

una evolución positiva y podrá crecer el uno coma ocho por ciento estimado este año insisto en que somos prudentes

amargarle su sonrisa bienvenida sea es más lo que nos estaba preocupando es que el gobierno vasco en vista de las previsiones de la economía española

reseteando y modificando los números respecto al crecimiento de la economía vasca entiendo que usted estaba buscando un momento que

pero nos estaba preocupando porque entendemos que efectivamente

mismo ha dicho aquí está haciendo de tirón para la economía vasca y esto es precisamente en lo que yo le quería esta mañana incidir

personas que están precisamente industriales y agentes del sector en estos últimos tiempos hay algunos elementos de frustración en todos ellos comunes y uno es el hecho de que euskadi salga más tarde de esta crisis eso no entraba en las previsiones no entraba en las previsiones porque nunca ha sido así

lehendakari desde nuestro punto de vista es fruto de la actitud que está manteniendo este gobierno durante estos años esa actitud de gobierno de bajo perfil

han tomado la decisión de dejarse llevar dejarse llevar por la economía española que tire la economía española y eso tiene consecuencias

al país vasco no por delante como siempre hemos estado sino diluyéndonos y le voy a dar algunos de los datos que están reflejando esto

los quintos por la cola índice de actividad del sector servicios segundos por la cola índice general de comercio al por menor

los quintos por la cola importaciones los sextos por la cola y usted me dirá sí pero con otras cifras efectivamente pero nosotros deberíamos estar mucho más por encima lehendakari

por toda la capacidad que tenemos en euskadi por eso lehendakari no creo que sean momentos de gobiernos de bajo perfil sino momentos de gobiernos que den

el foro en el que yo intervine y en el que hice referencia a la sonrisa en la mirada en positivo

dije que no me gustan las comparaciones con lo que son los datos de españa porque acaso no contribuimos nosotros a la mejora de la economía española mire

yo no voy a entrar en esas comparaciones puedo hablar del objetivo del déficit puedo hablar del menor endeudamiento

pero no voy a entrar en eso como lehendakari yo apuesto por un crecimiento de la economía vasca en la buena dirección

como tantas y tantas veces hemos dicho diferente modelo económico productivo de ahí también las características propias de la salida de la crisis

treinta años y hoy hemos soportado mejor la crisis estamos aprovechando estos años en los que se

para poder hacer otra política industrial adecuada a los nuevos tiempos

a superar una crisis global que ha ralentizado la economía en su conjunto

para incorporar nuevas tecnologías nuevos sectores y oportunidades de mercado estamos apoyando a la empresa cada día ese es nuestro esfuerzo

gracias presidenta buenos días señor lehendakari el gobierno lamentablemente se ha reunido en los últimos tiempos con

con etxerat asociación de familiares de presos de eta que y esto es lo importante sigue sin condenar a la banda terrorista y sin exigir su disolución definitiva e incondicional también se ha reunido con

condenado por delitos terroristas que no ha condenado a eta ni exigido tampoco su disolución en el caso de díez usabiaga según diversas fuentes

a la hoja de ruta del gobierno vasco en materia penitenciaria en la que muchos de sus contenidos no son competencia del ejecutivo autonómico en todo caso usted tiene que

encuentros y cuál es efectivamente su objetivo si asumió algún tipo de compromiso con el preso condenado por terrorismo díez usabiaga

de qué hablaron qué le dijeron a qué acuerdos se llegaron a qué acuerdos piensan llegar en el futuro

y democrática tengo que decir que a nosotros esos encuentros nos parecen absolutamente lamentables pero en todo caso una vez que se han producido usted tiene que explicar para qué se produjeron

señor maneiro utiliza usted lamentablemente en dos ocasiones una para referirse a personas pocas recomendables y lamentablemente ustedes también ya tienen su juicio hecho pero a pesar de tener su juicio hecho me pregunta

no se asumió ningún compromiso ni siquiera se planteó la entrevista no era para proponer compromisos ni para adquirirlos señor maneiro el objetivo era y escuchar trasladar la opinión del gobierno vasco en materia de paz y convivencia política penitenciaria y reinserción y también escuchar y recibir opiniones los puntos de vista del gobierno están recogidos en el plan de paz y convivencia en el programa hitzeman y en la propuesta

y han sido explicados en este parlamento y se le han sido explicados a usted mismo señor maneiro en un estado democrático

legal y constitucional la visita se sitúa en un marco de legalidad y normalidad lo anormal es no dialogar

y efectivamente el diálogo no resuelve los problemas per se pero lo facilita dialogar no significa ni legitima el terrorismo lo deslegitima dialogar deslegitima el terrorismo

más importantes de estas últimas semanas diálogo en colombia diálogo en irán diálogo en cuba también nuestra sociedad necesita mucho diálogo
hablar y escuchar hablar entre todos y escucharnos todos eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

sí gracias señor lehendakari yo creo en el diálogo en el diálogo entre partidos políticos democráticos entre personas decentes que en este caso concreto

en eso sí creo señor lehendakari aprovechó el gobierno para decir o para recordar a estas personas cuales han sido los delitos que han cometido recordaron ustedes a estas personas qué es lo que dice la legalidad vigente

recordaron a estas personas el dolor de las víctimas del terrorismo recordaron a estas personas cuáles son los requisitos perfectamente establecidos en la legalidad vigente para por ejemplo acceder a beneficios penitenciarios es mas pusieron ustedes como condición para reunirse con estas personas que condenen de manera

lo exigieron esto entiendo yo que es un requisito éticamente totalmente asumible que antes de reunirse con una asociación

su condena clara por los actos cometidos esto es lo que nosotros estamos diciendo y esto efectivamente no lo hizo el gobierno por eso me parece que es absolutamente

y que el gobierno no hubiera dicho todo esto a todas estas personas

recordar la legalidad vigente y hacer de esa forma pedagogía democrática eso es lo que el gobierno vasco tendría que haber hecho en el caso de que hubiera sido necesario

sigue sin condenar a eta y siguen justificando las acciones criminales de eta por eso me parece absolutamente inaceptable que esos encuentros se hayan podido producir

y las víctimas del terrorismo se sienten menospreciadas se sienten insultadas por esos encuentros se sienten abandonadas por este gobierno por qué ustedes no se reúnen más

cómo se encuentran las víctimas del terrorismo qué es lo que están pidiendo y tratar de atenderles más y mejor gracias eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro de todo lo que usted dice que el gobierno vasco debería haber dicho a estas personas y cree usted que no ha dicho

se ha leído la propuesta zuzen bidean se ha leído el plan de paz y convivencia del gobierno vasco

propuesta en el plan se integra todo lo que dice usted que no hemos dicho a esas personas con las que nos hemos reunido

más que las víctimas es inaceptable y es intolerable

que hace daño a las propias víctimas les envía el mensaje de que no importan y eso solo genera dolor en las víctimas y en política señor maneiro no todo vale

y arrojadiza además de vergonzoso es un factor de revictimización

a sacar a las víctimas de la contienda partidaria y tiene a su disposición el documento la relación del gobierno vasco con las víctimas a lo largo de la presente legislatura así titulado

ocupa tanto esfuerzo tanta dedicación tanta actividad y tanto personal como el de las víctimas

porque las víctimas representan para el gobierno vasco para este y para los anteriores una prioridad y un compromiso señor maneiro

creo que se ha caracterizado por también defender el diálogo para la resolución de un problema de convivencia también

que su líder de partido político la señora rosa díez podría hacer en relación al concepto de final dialogado de la violencia de la que ella misma era defensora cuando era miembro del gobierno vasco

rojo andrea zurea da hitza sí gracias

a los socialistas hoy nos gustaría salir de esta cámara conociendo por fin de forma clara y sin ambigüedades qué posición defiende el gobierno vasco sobre la técnica del fracking

euskadi cuál es la posición de su gobierno sobre la aplicación de la ley de hidrocarburos que ya está puesta en pista por el gobierno de españa y cuál es la apuesta energética del gobierno vasco para el futuro de nuestro país y confiamos

respuestas claras apuestas definidas y proyectos concretos que definan la política en este sector del gobierno vasco por eso hoy presentamos esta interpelación porque llevamos demasiado tiempo escuchando declaraciones contradictorias dependiendo de quién hable y en qué institución se encuentre

han firmado y protagonizado acuerdos negando el desarrollo de esta técnica e incluso hablando por voz de la plataforma que la niega y entre tanto su gobierno avanza

pero avanza chocando frontalmente con la iniciativa legislativa popular que han conseguido frenar más tiempo del que hubiera sido deseable en este parlamento

algunas dudas entorno a las necesidades energéticas de euskadi en torno al fracking al medioambiente

los socialistas vascos somos contrarios a la concesión de cualquier permiso para la exploración explotación de recursos energéticos sobre los que no se tengan plenas garantías ambientales por eso queremos que la ilp que ha llegado con la firma de más de cien mil ciudadanos y ciudadanas vascas

ofreciendo todas las garantías ambientales y eliminando cualquier riesgo actual o futuro para el medioambiente y la salud el fracking

no acaban de ofrecer garantías y de ahí la negativa al cheque en blanco la negativa a la puesta en marcha de una técnica que no ofrece esas garantías somos conscientes y conocedores

sabemos que no podemos prohibirlo de una forma genérica pero lo que permiten y desde luego no prohíben los tribunales es poner todos los límites que hagan posible esta técnica

plantear garantías medioambientales y actuar ajustado a sus competencias y aquí vendría la siguiente pregunta qué quieren hacer ustedes respecto a este tema sí o no

una será su posición siempre legítima esperemos que argumentada estudiada y analizada pero lo que queremos saber es cuál es su posición nuestra posición como he dicho es clara entendemos que es relevante porque va a garantizar atender la demanda de miles de ciudadanos lo que no terminamos de saber es lo que opina este gobierno y es lo que queremos aclarar

en cabeza de la manifestación la bandera que tanto ondeó en campaña la cambió cuando llego a ajuria enea por una alfombra roja que hoy pone para las empresas dedicadas a la fractura hidráulica

promueve campañas de divulgación favorable a esta técnica y como último gesto acompaña a través de su partido

la aportación del partido nacionalista vasco en el tema de la ley de hidrocarburos es que se establezcan impuestos añadidos que sirvan para compensar económicamente

los socialistas no queremos compensaciones lo que queremos es que esas compensaciones no sean necesarias y no haya que hablar de ellas por qué debe haber compensaciones si según ustedes

y decía que tenemos certezas algunas sobre nuestra debilidad energética

que esperamos tenga como resultado un diagnóstico más certero de carencias y también de oportunidades de momento sabemos que tenemos una dependencia exterior que supera el noventa y cinco por ciento de nuestro consumo energético sabemos que debemos reducir esa dependencia y buscar otras alternativas que surjan de nuestro entorno la pasada legislatura se aprobó la estrategia energética dos mil veinte

se propusieron estudios y se pusieron cautelas yo misma presenté

pidiendo todas las garantías ambientales para proyectos de exploración y explotación pero de entonces a hoy no hemos tenido una sola garantía de seguridad y esa falta de certezas junto con los indicios de pinchazos de burbujas en estados unidos que hacen sospechar

desde luego nos ponen a dudar y nos ponen en guardia por tanto tenemos certezas tenemos dudas y en ese escenario fijamos posición lo que no sabemos es la posición del gobierno vasco porque insisto quienes se presentaron a las elecciones prometiendo prohibir el fracking fueron ustedes quienes alertaron de la llegada del apocalipsis

hoy ni analizan ni tienen dudas suman su voto a quienes han proclamado abiertamente que su ley es para abrir

al fracking yo defiendo que quienes quieran esta técnica la defienda me parece bien

pero un pensamiento argumentado claro y transparente lo que me parecería bien y justo de cara a la ciudadanía vasca es que digan que digan lo que quieren hacer que digan lo que piensan que digan lo que defiende pero que lo digan en este parlamento y el congreso de los diputados porque no es justo escuchar las palabras que se dice

y luego sus diputados en el congreso de los diputados voten con el partido popular a favor de la ley de hidrocarburos que todos sabemos lo que pretende y pretende dar vía libre al fracking pretende dar vía libre a las prospecciones tienen un modelo

y a la hora de la verdad ustedes políticamente están apostando por el fracking es su posición no la comparto pero me parece legítimo que lo defiendan lo que no me parece justo es que mientan a la ciudadanía o más que mentir oculten la información a este parlamento han venido a comparecer en diferentes ocasiones

por petición propia han venido personas que trabajan en el eve y han venido personas que trabajan

y cada vez queda más clara la línea por la que apuesta su gobierno y lo que me parece justo es que lo digan claramente defiendan y por fin nos expliquen cómo lo van a llevar a hacer

y cuándo van a empezar a hacerlo porque a lo que me niego un gobierno se diga una cosa y se haga la contraria porque la cuestión en el sentido del voto del pnv en el congreso la cuestión es que ese partido su partido

afecta a los ciudadanos vascos y mucho y ustedes empiezan a ser los colaboradores mayores y más activos del partido popular en la política que va a beneficiar al fracking

pero ya queda muy pocos días para ver exactamente qué es lo que quiere el pnv en forma de enmiendas a la iniciativa legislativa popular y desde luego estamos deseosos de conocerlas

los elige cada cual y desde luego todo es legítimo si se hace dentro de los valores democráticos pero cuando uno está en casa cuando uno gobierna y tiene responsabilidades políticas

la motivación las consecuencias y los pasos a seguir de lo que va a condicionar la política vasca en un ámbito en el que muchos ciudadanos ya han dicho que están radicalmente por eso le pido claridad los socialistas vascos no vamos a propiciar una ley que no sea útil y desde luego que no sea legal porque regule lo que no puede regular pero seremos somos agentes activos para exigir el máximo de garantías ambientales que impidan en la práctica esta técnica en euskadi

y a la vista de que su consejera no nos ha aclarado nada en múltiples ocasiones que ha venido a la cámara queremos saber cuál es su posición como lehendakari como responsable del gobierno sobre este asunto y en concreto sobre la afección que va a tener para euskadi la ley que avala el partido nacionalista vasco para el conjunto de españa porque no podría entenderse el voto del pnv en el congreso de los diputados con una posición diferente

porque eso ya sería un escándalo aun mayor lo que a mí me parece es que ha llegado el momento de hablar claro

porque hay una iniciativa legislativa popular sobre la mesa cada vez se van más abocados a decir lo que opinan porque llegan iniciativas concretas al parlamento vasco

un plazo de enmiendas respecto a una iniciativa que planteó el señor maeztu respecto al fracking pero cuando llega la hora de hablar en comparecencias

sí o no que es lo que pide este parlamento que nadie va a criticar su posición más allá de lo que unos defendamos ideológicamente pero lo que podemos criticar es que ustedes nunca hablan claro respecto a este tema

y usted señor lehendakari por mucho que se niegue a reconocerlo usted empezó una campaña electoral autonómica negando la explotación y la exploración si el gobierno vasco lo liberaba usted
y hoy estamos como estamos y es lo que usted debe explicar a los ciudadanos eskerrik asko rojo andrea

señora rojo como usted terminaba la intervención como todo queda perfectamente escrito efectivamente le diría que lea la intervención y lo que decía el lehendakari en campaña completo completo de la primera palabra de la frase

no se quede en la coma intermedia por favor porque eso desde luego trastoca toda la intervención

me pide que aclare la posición del gobierno vasco y luego mezcla con distintas intervenciones yo le voy a decir la posición del gobierno no es la primera vez que usted nos la solicita y como insisto todo queda escrito tal y como usted ha dicho en la última de mis intervenciones

en comisión creo que quedó meridianamente clara la posición del gobierno vasco una decisión que no tenga usted ninguna duda siempre está guiada por el interés público por el aval técnico y el máximo respeto a las exigencias medioambientales

que es usted la máxima garante y su partido de las condiciones medioambientales

creo que somos desde luego defensores de esas garantías pero no hay nada nuevo en lo que estoy diciendo ahora pero dada la preocupación que se está suscitando ante el posible escenario también lo decía usted por la nueva ley de hidrocarburos que se está debatiendo todavía quiero recordarle en el congreso de los diputados

me gustaría subrayar algunos aspectos sustanciales de ese debate

como ejecutivo al gobierno vasco en primer lugar para empezar este gobierno pero también a los anteriores les corresponde la obligación de investigar

y valorar los recursos tanto naturales como energéticos en este caso de los que dispone el país se trata de una obligación de todos y cada uno de los gobiernos quiero recordarle que en la anterior legislatura cuando gobernaba el señor patxi lópez así se hizo también por tanto su postura

conocer los recursos y valorarlos supone investigar por supuesto porque sin investigar y conocer lo que hay tomar posiciones apriorísticas y adoptar decisiones

investigar para conocer y conocer para decidir y repito exactamente lo que dije en la última de mis intervenciones en comisión esa es la máxima guía

y que guía la tarea con todas las herramientas que tenemos para ello en este gobierno y sería desde luego una irresponsabilidad renunciar a este conocimiento

que hasta hace pocos días estaba absolutamente en contra de hacer nada y ha dicho

porque conocer es poder tomar una decisión hace ya más de treinta y dos años que se autorizó al ente vasco de la energía a crear

como una herramienta de nuestro autogobierno para explorar explotar en su caso hidrocarburos líquidos y gaseosos la trayectoria que ha realizado en ese camino desde luego ha sido ejemplar

en tercer lugar se ha referido usted a la argumentación al voto a favor del pnv

este supuesto apoyo no ha sido tal lea usted la trascripción de la comisión

tramitación y discusión y así lo va a estar en los próximos meses

como es el papel en el mercado de gas y desde luego vuelvo a retirar que el proyecto de ley está tramitándose y vamos a trabajar en ese debate y en esas posibilidades de negociación

en cualquier caso señora rojo creo que debe analizar el borrador con un poco más de rigor porque la ley de hidrocarburos que se está tramitando no es otra cosa que una modificación de la ley existente

hipotéticos beneficiarios derivados de una hipotética fuente de suministro de cualquier tipo cuya titularidad resida en el estado

este tema no le guste porque consideramos que en cualquier caso cualquier tipo de recurso sea energético o no por el cual un privado se vaya a beneficiar que sería interesante que los municipios del entorno también se vieran beneficiados en cuarto lugar nuestra posición es muy clara con respecto a la extracción de gas natural no convencional a su análisis a su investigación a su exploración como lo es

se deben analizar todas las alternativas posibles valorar sus posibles impactos económicos y por supuesto medioambientales respetar toda la normativa conocer y decidir en consecuencia y los equipos técnicos del gobierno

deberán considerar si el estado actual de las tecnologías que existen hacen factible y segura la posible investigación

debemos asegurar que eso es así y en su caso y si así se decidiera poner en práctica alguna de las situaciones pero insisto tenemos que

usted me habla como si estuviéramos a las puertas de iniciar una extracción de gas no convencional y no es el caso quiero llamarle la atención de que usted está hablando de

y todavía estamos en una fase no previa sino preliminar estamos haciendo los estudios de impacto ambiental que permitirían en su caso una posible exploración pero es que estamos llevando al debate a un lugar en el que no está se lo dije en la comisión es que puede ocurrir que ese estudio de impacto ambiental puesto a la luz pública y analizado por todas las partes interesadas

luego no vayamos al tercer paso cuando todavía estamos en el paso cero vamos a ser rigurosos todos y vamos a llegar el debate a donde está

se prohíbe esa exploración de hidrocarburos eso sí hay directivas y normativas que regulan cómo se debe hacer qué respeto a la normativa medioambiental hay que tener qué recomendaciones se realizan y todo ello está siendo considerado por este gobierno están hablando ustedes insistentemente además de una evaluación

que no desde este gobierno únicamente en todos los anteriores desde el ente vasco de la energía se está aplicando de forma sistemática

todos y cada uno de ellos una evaluación de impacto ambiental de estas características resumiendo por tanto no estamos en una situación en la que estamos votando a favor de la ley de hidrocarburos del estado español porque todavía estamos en debate y en cuanto a lo que se refiere a la actuación del gobierno vasco estamos evaluando y haciendo una evaluación de impacto ambiental rigurosa

no en ninguna otra tomemos entre todos las decisiones en el momento adecuado

y por supuesto se lo dije en aquel momento en el debate de la iniciativa legislativa popular evidentemente

pondrá las enmiendas correspondientes analizará su posición y el gobierno analizará lo que dice esta cámara por supuesto pero a día de hoy nuestra posición ha sido coherente durante todo este tiempo y por favor no nos lleve a la fase de explotación y no confunda no estamos ahí

ni de lejos estamos realizando el estudio de impacto ambiental riguroso como toda la cámara lo está exigiendo analizando todas las posibilidades que existen eso nos lleve a una negativa luego no debatamos y no llevemos

respecto a la dependencia energética por terminar efectivamente tenemos una dependencia energética impresionante y tenemos por tanto la obligación como gobierno de analizar posibles recursos

hidrocarburos gas en este caso como transición que también lo he dicho en más de una ocasión como un modelo de transición y medidas de eficiencia energética que hagan que tengamos

y lo han sido desde hace mucho tiempo no los hemos modificado adaptado a la tecnología existente sí pero eso son los tres pilares en estos momentos eskerrik asko eskerrik asko

sí gracias presidenta mire señora tapia el debate del fracking usted me puede hablar de en qué momento administrativo se encuentra pero en qué momento político está el debate del fracking aunque no le guste no lo marca el pnv al resto de la oposición

y usted sigue insistiendo una y otra vez no es que no estamos en otra explotación

el partido nacionalista vasco está a favor sí o no de la explotación del fracking después de que pase la exploración porque mire

me he leído todas las intervenciones porque he participado en todos los debates desde que este tema salió en el parlamento vasco hace seis años me he leído también las intervenciones de su compañero de partido en el congreso de los diputados el día de la votación en el congreso

le queda un proceso de debate pero la posición que marcó el partido nacionalista vasco léase usted la intervención entera del portavoz del partido nacionalista vasco en el tema dejó meridianamente claro que el partido nacionalista vasco está a favor de que la ley de hidrocarburos que lleva el señor soria en el congreso salga como lo quiere el partido popular y será legítimo políticamente pero díganlo pero dejen de marear la perdiz

lo que opinan ustedes de este país es que no les pedimos nada más

conocer para decidir claro también conocemos que la energía nuclear es solvente y no la queremos ustedes tampoco

pero es que no queremos la técnica porque sabemos lo que está pasando

es que francia dice qué dicen todos los estudios después de la explotación del fracking en estados unidos qué dice

y para tomar un criterio concreto y responsable hay que leerlo todo pero todo de todos es verdad que el señor patxi lópez fue a estados unidos la famosa foto del casco y dijo lo que dijo claro y por eso entendió que tenía que intentar estudiar qué había

a hoy es que hay muchísima más información de la que teníamos al principio es que todos los informes científicos y técnicos dicen lo contrario pero ustedes estaban en la oposición

pero es que entre tanto sus compañeros de oion en rioja alavesa han presentado una enmienda en boca de fracking ez que dice lo que dice

y ustedes creo que tienen que empezar a dar respuesta por otra parte no soy la máxima garante del medio ambiente

eso sí lo tengo claro y aquí hablo como natalia rojo a nivel personal

que le da exactamente igual lo que diga este parlamento y lo que diga la diputación foral de álava porque no va a cumplir el mandato parlamentario

creo que más al partido socialista y más respeto a las decisiones parlamentarias ustedes cuando gobiernan intentan hacer lo que quieren y cuando están en la oposición siempre

lo que he dicho de las declaraciones del señor urkullu en campaña electoral le recomiendo sobre todo al señor lehendakari

de un ciudadano que escribe y comienza su carta al director diciendo no habrá en el país vasco ni exploración ni explotación del subsuelo sobre el fracking eso dijo el señor lehendakari en campaña previa

el paso del tiempo ha dado perspectiva suficiente como para determinar que en el reparto de papeles el lehendakari se reservó el papel de poli bueno

como lo demuestran algunas manifestaciones y hechos posteriores de las primeras según la consejera entrecomilla no existen evidencias negativas sobre la utilización de esa técnica la misma consejera que anteriormente había dicho que no estaba de acuerdo con el desarrollo del fracking los vascos tendremos la gasolina más barata si finalmente obtenemos gasopetroleo ambas manifestaciones coinciden en la idea de tratarnos a los ciudadanos como analfabetos funcionales

y acaba diciendo otra historia es la del lehendakari que a partir de su promesa incumplida

dejando que la poli mala de la cara mire señor lehendakari el tema del fracking creo que es tan importante como todos los que se tratan en este parlamento si el grupo socialista ha dirigido la intervención a usted

y entendíamos que usted como máximo responsable es quien debe ya dar respuesta a qué es lo que van a hacer entendemos y nos parece legítimo el papel de la señora tapia pero creemos que usted vuelve a escurrir el bulto con el tema del fracking

pero el partido nacionalista vasco en madrid con el partido popular eskerrik asko rojo andrea jaurlaritzaren ordezkaria tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea bueno como volveremos a reiterar los argumentos voy a tener que reiterar yo los míos también en primer lugar

podemos estar mas o menos de acuerdo y totalmente respetable evidentemente léase lo que decía el lehendakari por favor desde la primera palabra

léaselo completo y no me lea la carta al director sino la declaración del lehendakari eso en primer lugar

hablábamos en aquella famosa comisión que parece que no hablo suficientemente claro a mí me parece que sí pero bueno parece que no hablábamos de una serie de estudios y usted ha hecho referencia a uno uno que aparece en estados unidos el último que me lo he leído por cierto se los lee también este gobierno todo y allí no hay nada contundente ni excesivamente aclaratorio pero hay muchísimos estudios y los analizamos todos porque nos interesa tanto como a usted

eso de que usted es más medioambientalista que yo y en base a que qué nos mide a usted más medioambientalista que a mí porque me encantaría saberlo tengo manías soy ingeniero y me gusta saber una serie de medidas entonces usted me dirá en qué basa esa afirmación

toma decisiones más medioambientales que el pnv bien y además usted es más que yo estupendo dígame usted en base a qué porque desde luego

no sé en que lo basa es imposible hacer una declaración de esas características desde luego riguroso cero si toda su intervención ha sido igual de rigurosa que esa afirmación pues no nos vamos a poder creer nada de lo que usted ha dicho en tercer lugar a lo largo de las sesiones

por última vez hay opiniones y se han dado opiniones a favor y en contra

el debate sereno que hay que realizar eso es de lo que hay que hablar y desde que el señor patxi lópez estuvo allí con el casco como usted bien decía hasta hoy

pues a hacer lo que tenía que hacer hacer un estudio medioambiental riguroso de una posible exploración si se diera el caso y se decidiera pero para eso hay que hacer una serie de trámites no basta con que yo venga aquí y haga una declaración yo como gobierno en este caso representando al gobierno tengo la obligación de hacer ese estudio y eso es lo que hemos hecho primer paso a usted le gusta que me pronuncie del último pero es que primero hay que hacer el primero

es lo que hay hacer y un gobierno tiene que hacerlo y la posición política lo definirán

de la ilp usted me pregunta como gobierno ni como miembro del pnv ni como miembro del parlamento ni me está preguntando como miembro del ayuntamiento de oion me está preguntando como gobierno y yo le respondo como gobierno estamos ante un debate que debería prevalecer

medioambiental y económico con todas sus vertientes y a eso estamos dispuestos y eso es lo que estamos haciendo y respetaremos como siempre lo hemos hecho porque también me ha llamado muchísimo la atención usted me dice respete las decisiones de este parlamento acaso no las hemos respetado acaso no estamos haciendo el estudio medioambiental que requiere

sacando el dedo y decidiendo lo que me apetece creo que tenemos que hacer estudios rigurosos tal como se está haciendo en la comisión ese es nuestro compromiso eso es lo que tenemos que hacer y por favor vamos a ser un poco rigurosos son decisiones difíciles sí como usted bien decía

hay toda una escala de grises que hay que valorar en cuál estamos y en qué condiciones

en este caso creo que somos personas que sabemos analizar que sabemos estudiar y tomar decisiones en función de ese estudio y ese análisis riguroso insisto creo que usted no quiere ser igual de rigurosa que la afirmación que ha hecho respecto de usted y de mi creo que quiere ser rigurosa con los estudios que se hacen hagámoslos y por favor léase la ley de hidrocarburos del estado que no hace referencia al fracking

de la ley de hidrocarburos existente analícela usted por favor con rigor y seriedad eskerrik asko eskerrik asko tapia

bidea bera erabakitzeko eskubidea dela hasta el momento ese debate en lo que se ha traducido en el marco que nos compete

que básicamente en nuestra opinión ha tenido

precisamente y de que no se pudiera llegar a un acuerdo político se ha pretendido alargar en el tiempo esa fase para que no se produjera dicho acuerdo político

en el pnv ha gustado lo que ramón jáuregui dijo en dicha ponencia y que se advierte cierta sintonía con lo que se dijo entonces sinceramente en eh bildu tenemos mucha más sintonía con lo que el otro día dijo el lehendakari juan josé ibarretxe inork ez dezala gaizki pentsa

de setenta y cinco son suficientes para considerar un acuerdo democrático o el pnv el lehendakari considera que es insuficiente esa mayoría

era que había que preguntar a la sociedad vasca sabemos lo que piensa cada partido político

en la ponencia de autogobierno pero sabemos lo que piensa cada partido político sabemos que ni el partido popular ni el partido socialista están a favor del derecho a decidir y que nunca como ellos mismos se han encargado de subrayar y pensamos que hay otros partidos políticos otras formaciones

y otras que a día de hoy están fuera de esta cámara que sí que están a favor del derecho a decidir en este país

queremos preguntarle nosotros también eh bildu también quiere preguntarle a la gente queremos saber lo que piensan en este caso las alavesas

qué piensa el país sobre esta cuestión y como el lehendakari ibarretxe nosotros también estamos a favor de que se intente la negociación hasta la extenuación con el estado español

honesto de negociación por nuestra parte para demostrar básicamente al concierto internacional que ese estado español no tiene ninguna voluntad democrática

y de esa forma cuando este país mediante sus instituciones declare unilateralmente la independencia porque es

el estado español como a cataluña en ese momento seamos reconocidos como estados libres independientes

y otros estados en ese sentido consideramos que quizás sea el momento de

la propuesta del nuevo estatuto es el momento quizás de desempolvarlo

no décimos desde eh bildu ni mucho menos que esta tenga que ser la estación término pero sí que teniendo en cuenta que esto ha sido aprobado por mayoría absoluta en esta cámara

para poder empezar a hacer este camino y en ese sentido pensamos que también además hay otros instrumentos como el propio señor ibarretxe aportó en los borradores de loyola o incluso las propias potencialidades

erabakitzeko eskubidea eta adibidez zehatza jarriko dut anteayer draghi anunció la próxima reforma laboral que nos va a tratar de imponer el gobierno de rajoy y nosotros coincidimos bastante en la valoración crítica que hizo de la anterior reforma laboral el consejero toña en el día de ayer si estamos de acuerdo en este país y hay una mayoría suficiente que dice que estamos en contra de esas reformas laborales que nos quieren imponer que nos precarizan la vida y que hacen

no décimos y construimos nuestro propio marco de relaciones laborales para que no se pueda aplicar en este país

ni un gobierno municipal ni un gobierno foral en contra del derecho a decidir en este país queremos y necesitamos municipales y forales en manos de fuerzas políticas comprometidas con el derecho a decidir para que se conviertan en palancas del proceso soberanista

dice usted he leído en algún sitio que gentes del pnv están satisfechos o se sienten reconocidos en lo que el señor ramón jáuregui dijo aquí en la ponencia de autogobierno yo también lo he leído

y lo he leído de un columnista de un medio de comunicación

no diga he leído en algún sitio que gentes del pnv

y no venga usted aquí a hacer el juego de decir no quiero contraponer al lehendakari ibarretxe con

y ha trufado toda su intervención de las citas al lehendakari ibarretxe arraiz jauna duela zazpi hilabete aurreko

eta ditugun aukerak baliatzeko sí tenemos un programa y tenemos un compromiso un compromiso en el espacio sí en el espacio y en el tiempo

ustedes reclamaban un espacio de encuentro entre todas las fuerzas políticas vascas para avanzar en este nuevo tiempo cuando se constituye la ponencia y fija su calendario de trabajo

toman parte escuchan y son escuchados pero ahora de repente a ustedes les entran las prisas y quieren cambiar la hoja de ruta usted comprometió moverse

lo que se le ha ocurrido para dar sensación de movimiento es que nos movamos todos los demás pero

la ponencia de autogobierno es el espacio y tiene su tiempo hay una hoja de ruta y hoy lo que hay que hacer es seguirla

vascos con diferentes sentimientos de pertenencia y esto es también lo que se consiguió en el preacuerdo de loyola en el que precisamente estuve yo señor arraiz

tenemos la oportunidad de abrir un nuevo tiempo si existe voluntad política podemos hacer realidad y materializar la plurinacionalidad del estado español que este nuevo tiempo en esta nueva transición debe ser posible el ejercicio pactado del derecho a decidir tal y como ha sido posible en europa hace muy pocos meses

y a nuestro futuro en el año mil novecientos setenta y nueve en el año mil novecientos noventa en el año dos mil cuatro por cierto no con todos los votos del grupo parlamentario al que usted hubiera pertenecido y también hace solo tres meses

hemos votado en cada decisión adoptada soy y somos partidarios

y ahora volvemos a tener que volver a tomar decisiones precisamente lo que la ponencia de autogobierno está planteando es una evaluación del camino recorrido

y no renuncio a este objetivo menos en una cuestión que considero estructural

menos con la ponencia de autogobierno en marcha lo he dicho en más

volver a intentarlo no renunciar volver a intentarlo significa propiciar el entendimiento y el acuerdo y en nuestra cultura entiendo que gobernar es acordar

circunstancias que nos son más favorables todas las personas aquí reunidas conocemos la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca

de superar el contencioso político vasco la voluntad mayoritaria de hacerlo desde la integración de diferentes sensibilidades ideológicas también ustedes defienden esto por lo menos en algunos escritos suyos que conforman una sociedad vasca plural

un acuerdo incluyente entre diferentes sensibilidades políticas del país un acuerdo que sea ratificado por la sociedad vasca y respetado

igual hay que ir uno a uno preguntando porque igual no somos cuarenta y ocho

amaitzeko zuk aipatu duzu que se puede abrir un nuevo tiempo no

el nuevo tiempo está abierto ya está abierto y corremos el riesgo de que se convierta en viejo tiempo

creemos que hay que aprovechar la oportunidad nunca nadie ha contado con una oportunidad como esta

solo es cuestión de voluntad política y la nuestra vuelve a estar encima de la mesa eskerrik asko arraiz jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

sobre la aportación o sobre la base de las aportaciones de todos porque creo sinceramente que este es el signo de los tiempos acordar

en algunos momentos yo lo que pido es que

últimamente también han reeditado porque además de nos vamos a mover usted adelantó también que iban a comenzar

un nuevo vocabulario y yo le propongo que sustituyan la insubordinación de las instituciones por el respeto y el compromiso institucional yo le propongo que sustituyan el concepto de los actos de desobediencia e insubordinación

yo le propongo como le he dicho que sustituyan el proceso revolucionario unilateral por la construcción nacional y social en el día a día

y como le he dicho ya hay una hoja de ruta y lo que hay que hacer es seguirla bukatzeko beraz

y esa es una de las pretensiones con las que hacíamos esta interpelación en la anterior

también se hablaba del movimiento y de otra serie de cuestiones yo creo que vienen también con este tema no voy a seguir con el tema anterior pero

que servirían para este punto también nosotros somos claros una de nuestras pretensiones es volver a hablar

conformamos con hacer de esta cámara únicamente un espacio de confrontación donde nosotros pongamos encima de la mesa

porque parece que en la sociedad está cogiendo cuerpo y dimensión la oposición al ttip pero como digo no queremos

encontremos una fórmula que nos permita cotejar con la sociedad vasca con aquellos a los que representamos cuál es su opinión

de su vida futura y lo hacemos hoy porque no lo pudimos hacer en una ocasión anterior y esta vez no fue por nuestra voluntad que además en esta ocasión coincide con el día internacional de la lucha campesina que también está haciendo de la jornada de oposición al ttip uno de sus motivos fundamentales en este día

la gente que apuesta por la soberanía alimentaria y la lucha campesina quienes

va a haber una jornada europea de acción global contra el ttip en las diferentes capitales europeas también

pero es que además también en este parlamento más allá de los sindicatos que han venido a posicionarse de manera clara rotunda sin ambages en contra

de formar parte de nuestra visión cosmogónica de la sociedad como la gente del foro rural mundial que les ha dicho

y desde luego muy certera de lo que es su futuro por tanto y en la medida que existe todo este tipo de rechazo y de respuesta no creo

nos movemos en la calle en las movilizaciones y desde luego nos movemos con la sociedad y es cierto que el ttip no arranca hace unos días

arranca en el dos mil trece y arranca aunque de manera oficiosa con una ronda de negociaciones con unas declaraciones de alguien

del mayor fondo de capital riesgo del mundo de ray dalio cuando dice

sea menos saludable lo dice en davos que tampoco es un lugar poco significativo y por eso creemos que en esta cámara se tiene que tratar porque con independencia de cuál sea la posición que uno pueda tener con respecto al ttip parece que quienes quieren imponer el ttip

siguen defendiendo una comunión de intereses con esta

esta élite económica que gobierna el mundo y creemos que eso no es democrático

no se expresa en términos democráticos y como creemos que en esta cámara sí todos queremos expresarnos en términos democráticos creemos que tiene que producirse este debate

hemos hablado en otra ocasión del ceta hemos hablado del tisa hemos hablado

y que ese orden sea inamovible y eso es lo que realmente nos preocupa porque a nosotros en la confrontación de modelos no nos importa perder nos arriesgamos a perder

veces lo de perder alguna vez también hemos ganado lo que nos preocupa de verdad es que alguien trastoque las reglas del juego se salte la democracia dé un golpe de estado a la democracia

su orden social y eso es lo que las transnacionales están haciendo lo que las grandes

y lo hacen sustituyendo la democracia por la corpocracia por aquella que determina que las personas somos unidades de consumo eso es lo que importamos a las grandes corporaciones y todo eso es lo que está haciendo que se consagren tratados como este porque quizás se nos hable de que todas las amenazas que nosotros vemos en el ttip no son del todo ciertas

de que lo que tiene que ver con la privatización de los servicios públicos con la sanidad con la educación con el propio agua como bien común

y que probablemente me señalen que no va a venir en el ttip y que va a haber salvedades para que en ttip no se pueda hablar de eso

que es un acuerdo paralelo que está en la doceava ronda de negociaciones y que tiene tres cláusulas que son dignas de mención una nos sonará a todos pero por el nombre no porque conozcamos el detalle se llama la cláusula del trinquete

hacia una lectura liberalizadora ninguna de las medidas posteriores puede quebrar ese objetivo

nunca en un camino reversivo en un camino de reintegración o de republicación esa es una de las cláusulas del tisa que se negocia en paralelo del ttip el otro se llama la lista negativa

forman parte del acuerdo salvo las que se excluyan de manera expresa pero quedando incluidas también aquellas que hoy no son detectables como áreas de comercio es decir las nuevas tecnologías hace quince o veinte años probablemente no eran detectables como un área de comercio en la medida en que lo son ahora

eso también sería objeto susceptible de estar integrado y el otro servicios públicos estrictos así se llama servicios públicos estrictos

la administración pública y que no puede prestar ninguna otra eso es lo único que quedaría excluido de estos acuerdos comerciales de liberalización como el tisa y a qué me estoy refiriendo pues al ejercitó que probablemente

o de la policía en cierta medida o de ciertos aspectos técnicos de la aviación que todavía se reserva era ya no tanto un ejemplo de eso por tanto esa es la realidad en la que nos estamos moviendo y como le decía

que suponen un ataque directo a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras un ataque derecho a nuestra salud un ataque derecho a nuestro futuro y un ataque directo a la soberanía de los pueblos porque

y qué no van a poder hacer nosotros lo que queremos es interpelarle a usted lehendakari

una reunión de comunidades autónomas del

a favor del ttip o señalando las bondades traigo por aquí un recorte para que no me pase como a mi compañero

pero el titular es urkullu defiende el tratado de libre comercio entre la ue y estados unidos de ahí la interpelación si usted tiene esta posición lo que nosotros queremos saber es qué piensa hacer su gobierno

en todo este trayecto porque lo que si sabemos es lo que hizo el pnv en el dos mil catorce supongo que igual que lo he leído yo ustedes lo conocerán mejor yo me ahorro

pero en ese momento el partido nacionalista vasco con el partido popular con el partido socialista con votó en contra de una iniciativa de izquierda plural para promover un referéndum

las razones que argumentaron pues eran que no era el momento ni la oportunidad pero

ya tenemos una experiencia con la otan aunque el resultado fuera positivo en la respuesta de los ciudadanos negativo en lo que tiene que ver con la audiencia o con el respeto

ya tenemos un precedente porque no se plantean hacer algo similar con

no digo ya como realidad europea porque también conozco que podrá ser o no puesto a consideración de los estados en función del carácter exclusivamente comercial o no

decidirán que ya no hay que volver a pasarlo por los

por las cámaras de los diferentes estados sino que ya valdría con el mandato imperativo que en su momento le otorgaron y que también el congreso de los diputados español hizo a mí me interesa qué vamos a hacer nosotros y nosotras qué va a hacer este gobierno para abrir ese debate para abrir esa participación

informar a la ciudadanía y para que la ciudadanía pueda decidir porque eso es democracia seguramente en eso estaremos de acuerdo la democracia es acordar dialogar consensuar

de escuchar a la ciudadanía y si no de respetar lo que decida nosotros estamos dispuestos a respetar

y a pesar de que no hay plazo para alcanzar un acuerdo se está retrasando es cierto

pero que una vez alcanzado el acuerdo deben ser los estados miembros y el parlamento europeo además quien lo apruebe los defensores del acuerdo argumentan que esto ayudará a crear más economía más empleo se produce una situación win win

cada uno tendrá que poner de su parte para que esto sea así y contribuirá a la reducción de tarifas y a la reducción de barreras arancelarias a ambos lados cuáles son las potenciales ventajas del acuerdo según estimaciones

mencionaba usted mismo este centro el pasado año cuando creo que estábamos

dice que un ochenta por ciento de los potenciales beneficiarios de este acuerdo dependerán de la capacidad que ambas partes tengan de analizar la normativa existente y de evitar que se produzca una duplicidad

que aquellos productores aquellas empresas ubicadas en europa por tanto en euskadi que es de quien estamos hablando no tengan que superar una duplicidad normativa la europea y la americana

una continuidad en el liderazgo de cada una de las partes de la normativa que está realizando pero una facilidad para entenderse para interconectarse si estamos hablando en europa

en transporte no solo ferroviario viario sino también energético y hablamos de analizar y de interconectar nuestros países con una normativa que sea

mejorará la competitividad global de ambas partes reduciendo esas barreras que en este momento se están produciendo aumentará la competencia y ayudará a fortalecer a nuestras empresas sobre todo a las pequeñas y medianas las que son realmente castigadas por esta duplicidad de normativa

a disminuir las garantías de lo que se está realizando en este momento ni que vamos a rebajar la normativa no es eso el impacto para euskadi también sería positivo por qué porque euskadi siempre ha ganado cuando hemos accedido a un mercado más global y a un mercado mucho más simple y más accesible para todo un mercado más abierto

muy especialmente en sectores como la automoción la máquina herramienta el equipamiento de transporte la energía no olvidemos además que los estados unidos son el tercer país

del proceso la comisión ha procurado realizar un esfuerzo pero no suficiente en cuanto

quizás no ha escuchado suficiente lo que se ha realizado se ha creado una página web se han publicado los informes

también han hablado pero en definitiva no es suficiente la propia comisaria lo está diciendo y quiere mejorar esta situación el acuerdo requiere

información y dejar que todo aquel implicado hable eso es cierto por ello el gobierno vasco en la reunión del comité de las regiones de febrero de este año ha realizado una propuesta ya

y que deberán presentarse además de forma comprensible y de forma limpia y oportuna significa informar a entes regionales a entes locales de todas las directrices de las negociaciones que se están llevando acabo e informar a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la unión europea

tenemos que considerar que las negociaciones sobre este tratado incluye ámbitos que recaen además en algunos casos como ocurre en euskadi

y los parlamentos correspondientes deberán hablar la posición de euskadi se ha planteado en ese comité de las regiones en febrero de dos mil quince

se lo voy a detallar en primer lugar tomando en consideración la importante dimensión regional y local del acuerdo se solicita a la comisión europea que permita la entrada en el grupo consultivo sobre ese documento en su calidad de asamblea de representantes locales y regionales de la unión europea para garantizar la participación

locales y regionales también municipales en segundo lugar habida cuenta del alcance

de este posible acuerdo debemos asegurar el control democrático de las negociaciones por supuesto y por consiguiente se solicita además a la comisión que garantice que se lleva acabo todo el proceso con la máxima transparencia significa hacer públicos todos los documentos lo hemos dicho de forma comprensible sí

y tener en cuenta todas las participaciones de todos los agentes implicados y por último se subraya

sí también a cada uno de los veintiocho estados miembros pero también debe estar sujeto a la aprobación de los gobiernos parlamentos y cámaras locales

por último además el gobierno vasco en ejercicio de la transparencia que reclama va a impulsar la celebración de sesiones informativas con todos y cada uno de los agentes de la sociedad civil de este país esa es nuestra voluntad y usted me hacía referencia a uno de los sectores implicados que es cierto el sector agrario y el sector agrario es el más sí es el más afectado porque en estos momentos es cierto que de alguna forma existen una cierta calidad de proteccionismo de subvenciones en la unión europea que bueno

pero no es menos cierto que la política que se lleva a cabo en estados unidos del

nos está afectando muchísimo al resto de producciones y a la entrada

este tratado va a permitir facilitar todas esas actuaciones y en ese sentido

creemos como gobierno que es un tratado que va a ser interesante para nuestro desarrollo económico eskerrik asko tapia andrea matute jauna zurea da hitza

con la idea de señalarle las maldades de la posición contraria y vender las bondades

usted y yo al menos asistiendo como actores invitados a una película de matrix usted una realidad y yo veo la contraria yo no sé quién de los dos ha tomado la pastilla azul y quién la roja porque fíjese para usted

siemens se ofrece a urkullu para apoyar a las pymes vascas en su modernización

hay un subtitular que dice siemens y lakua empezarán de inmediato a trabajar de manera conjunta y quizás si alguien ve así el titular pueda decir bueno parece que están haciendo lo que tienen que hacer trabajar

aquí que es designado

para generar un comité científico de auditoría de la deuda griega y dice que siemens en el año dos mil nueve su labor fundamental fue gastarse más de cien millónes de euros en regalar dinero a los políticos griegos que no demostraron ser muy decorosos en el ejercicio y en el desempeño de su función pues uno empieza a preocuparse empieza a preocuparse un poco no por sus intenciones si no porque parece

de cómo influir en los gobiernos probablemente va muy en contra de lo que la ciudadanía espera de nosotros y de nosotras

y me ha hablado y me ha señalado los efectos positivos del acuerdo

yo creo que en esta cámara hemos tenido oportunidad de escuchar a mucha gente usted me hablaba del ejemplo que he puesto hoy del mundo rural si es que no he querido hacer una retahíla de todos los agentes sociales

que desde hace décadas desde hace décadas no se concita una pluralidad tan amplia en una plataforma en una campaña en contra de algo y esto se está consiguiendo con el ttip todo el arco sindical absolutamente todo prácticamente todo el arco asociativo desde la coordinadora de ongs pasando por todos los movimientos internacionalistas de cooperación ecologistas de mujeres todos

nos hemos vuelto catastrofistas no vemos las bondades que usted nos señala

es muy diferente a la que usted nos señala yo no digo que no lo señale

que es que cuando usted habla de el carácter similar a mercosur lo que podemos decir

cuando plantearon un acuerdo similar a este lo que querían era dejar de exportar personas para poder exportar mercancías la realidad a día de hoy es que siguen exportando personas y cuando digo exportar no lo digo en términos de

y no exportan mercancías apenas y que aunque crezcan mucho creo que

su realidad es que siguen empobreciendo y desestructurando su sociedad hacia dentro y eso no lo queremos para

tampoco lo querrá pero esa es la aplicación práctica de esos tratados comerciales para el socio más débil y supongo

divergencia en una realidad de tratado comercial con estados unidos al menos

supongo que ahí por mucho que nos vengamos arriba lo tendremos claro y no le he hablado de la cooperación regulatoria ni del isds usted lo ha hecho de alguna manera sigo manteniendo lo que he dicho en esta cámara y lo que han dicho todos los sindicatos

que la cooperación regulatoria lo único que hace es imponer una desregulación de los mercados también del laboral y por tanto precarizar las condiciones de vida del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas no quito ni una coma a eso

un insulto a la ciudadanía que haya gobierno alguno que la defienda porque es sustraer al ejercicio legítimo de la justicia

donde los intereses de las trasnacionales siempre salen bien parados y me parece bien que usted señale

esa información sobre lo que piensan hacer aquí no me parece mal pero yo creo que hace falta un referéndum y fíjese antes nos pedían que

yo no he venido a esta tribuna hoy a pedir insubordinación o insumisión al ttip en relación a otro punto pero que nos dejáramos de decir esas cosas en los textos para decir otras

aquí a plantear la insubordinación de este gobierno con el ttip me gustaría pero sé que está

lo que yo he venido a pedirle es que pregunte a la ciudadanía

y fundamentalmente con cosas que nos afectan tanto y no le he pedido eso porque realmente podría
ya que en irún su partido el partido nacionalista vasco firmó un texto que pedía la insumisión del ayuntamiento de irún al ttip eskerrik asko matute jauna

eskerrik asko presidente anderea bueno señor matute como en varias ocasiones hablamos usted y yo como en dos

sin ningún problema en cualquier caso está hablando de que la realidad es tozuda de que mercosur no ha cumplido lo que se esperaba de ellos realmente el pasado año junto con el lehendakari en octubre tuvimos ocasión de conocer de cerca la realidad mexicana de estar con representantes de su gobierno y creo que la lectura que hacían de ese tratado es exactamente la contraria de la que usted hace pero probablemente también allí habrá

todo tiene probablemente una serie de lecturas pero siempre hay una parte positiva y permítame que yo

como le he dicho se ha comprobado que euskadi cada vez que se ha liberalizado un mercado ha salido ganando su economía ha salido ganando eso es cierto y está basado en datos en cualquier caso hay una cosa que sí le quiero decir porque usted ha dejado veladamente una semiacusación o eso he creído entender que no me ha gustado nada

usted ha querido decir acaso que siemens ha venido a regalar algo a este gobierno

que siendo una empresa importante multinacional puntera puede resultar de gran interés para nuestra empresa colaborar y esa es la labor de nuestro gobierno hacer que nuestra empresa pequeña de un país de dos millónes de habitantes sea posicionado en el mapa desde luego a través de la mano de siemens si es posible por qué no

ha pretendido aquí trasladar y eso lo quiero dejar bien claro hablaba usted de un referéndum

creo que no lo decidió euskadi solo me da la impresión de que se decidió en otros niveles nosotros vamos a hacer todo lo posible como le he leído y además

evidentemente no tenemos ningún inconveniente en apoyarlo pero usted entenderá cuando no pide insubordinación tampoco nos pida cosas que no podemos hacer y no me hable de alguien

vamos a hacer las cosas con responsabilidad y allá donde podamos hacerlas plantear las cosas que podamos hacer

aquí tomemos una posición se lo he leído previamente la posición de este gobierno ha sido esa en el comité de las regiones por tanto vamos a hablar de las cosas que nos tocan y si euskadi está

en otras situaciones es porque nuestra economía está internacionalizada y ha ido al mundo no solamente a europa y también ha entrado en estados unidos con mucha dificultad por cierto

y un tratado que nos permita acceder a mercados importantes siempre será bienvenido con las máxima garantías por supuesto pero un tratado que permita que nuestro gobierno

generando riqueza y empleo que venga después a euskadi

siempre crear riqueza para después poderla repartir y si esto es bueno para nuestro país por supuesto lo vamos a apoyar eskerrik asko eskerrik asko tapia

sí muchas gracias presidenta señor lehendakari

sobre las actuaciones que el gobierno vasco piensa tomar de aquí en adelante para reformar y modernizar el entramado institucional vasco es decir si este gobierno va a hacer algo en relación a esta cuestión o va a seguir mirando a las musarañas y va a dejar todo exactamente como

durante las últimas décadas lo cierto es que han sido innumerables las ocasiones desde el año dos mil nueve

la necesidad de modernizar el entramado institucional vasco y en concreto la necesidad de reformar la ley de territorios históricos en innumerables ocasiones desde el mismo año dos mil nueve hemos traído diferentes iniciativas durante la noveno legislatura durante la pasada legislatura una iniciativa de upyd resultado posterior la realización de un estudio por parte del gobierno vasco sobre las ineficiencias y las duplicidades que el entramado institucional vasco provoca y la constitución de una ponencia que analizara posibles medidas correctoras y modernizadoras esta legislatura se ha repetido en la historia upyd presenta una iniciativa sobre la misma cuestión la necesidad de reformar la ley de territorios históricos y esta iniciativa tuvo como consecuencia la firma el veinticuatro de enero de dos mil trece de una enmienda transaccional

y el grupo socialista para la constitución de una nueva ponencia para estudiar las competencias de las diferentes administraciones públicas que actúan dentro del ámbito de la comunidad

nuevamente lo que nosotros consideramos indispensable que es la reforma de la ley de territorios históricos cada vez que upyd ha traído una propuesta en este sentido

o lo que se ha propuesto como alternativa es la constitución de una ponencia para que estudiemos dentro de esa ponencia qué es lo que supuestamente debería hacerse pero esas ponencias

tienen que tener continuidad en forma de acciones políticas en forma de decisiones políticas porque estas ponencias si no se mantienen en el tiempo y lo único que hacemos es filosofar sobre la cuestión pero las decisiones importantes se posponen a día de hoy todo está

debe pasarse como digo a los hechos y a las reformas de todas las leyes que sean precisas para modernizar y actualizar nuestro entramado institucional es

esperar más no podemos dar largas a esta cuestión el gobierno y en concreto el partido nacionalista vasco y el resto de partidos políticos no pueden seguir dando largas

es absolutamente indispensable y urgente en el pasado a la vista está no ha habido voluntad política para modernizar nuestra arquitectura institucional interna

la legislatura la voluntad de este gobierno para llevar a cabo ese propósito que nosotros como digo consideramos absolutamente inaplazable por eso le pregunto sobre los propósitos de este gobierno para actualizar y modernizar el entramado institucional vasco y en concreto

históricos que establece las relaciones y el reparto competencial entre las diputaciones y el gobierno vasco en nuestra opinión lo hemos repetido en innumerables ocasiones no es razonable que una comunidad autónoma como la vasca de apenas dos millónes de habitantes

cuatro parlamentos tenga cuatro gobiernos tenga tres políticas fiscales tenga tres haciendas o tenga doscientos cincuenta y uno municipios esto es inaceptable esto es un arcaísmo que debe modificarse cuanto antes y con el acuerdo obviamente del mayor número de partidos políticos posibles hay que modernizarse internamente además la llamada ley de territorios históricos facilita que se produzcan múltiples y graves ineficiencias duplicidades administrativas sobredimensionamiento de estructuras y conflictos interinstitucionales por lo que proponemos y propondremos nuevamente su reforma

en la historia pasada no pueden existir leyes sagradas la reforma de la ley de territorios históricos evidentemente no es la panacea que resolvería todos nuestros males pero sí creemos que es absolutamente indispensable llevarla a cabo obviamente a esta reforma deberían unirse otras como la aprobación de una ley la reducción drástica del entramado de empresas públicas que siguen existiendo o un proceso de fusión de municipios del tipo en que se ha hecho

europeos según un informe del anterior gobierno el complejo entramado institucional vasco genera incomodidades burocráticas y desigualdad entre los ciudadanos provoca

en la gestión de numerosas políticas públicas según aquel estudio tales ineficiencias y duplicidades nos supondrían algo más de cuatrocientos millónes de euros anuales un estudio realizado por el gobierno anterior que sin embargo y desgraciadamente no sirvió para convencer a una mayoría de esta cámara ni al gobierno

la lth y de profundizar sobre todas esas reformas pendientes este informe por lo tanto y sobre todo

acumulada confirman que este entramado es un disparate en su configuración actual y que es urgente reformarlo profundamente

sino también y sobre todo para modificar y clarificar el reparto competencial y proceder a eliminar o redimensionar las instituciones que se demuestren innecesarias

como responsables públicos tratar de impulsar las reformas que sean necesarias para alcanzar la mejor estructura institucional posible aquella que sea más eficaz

que mejor facilite la prestación de más y mejores servicios la más viable la más razonable la más sostenible la más justa e igualitaria

entre administraciones se trata y es lo que proponemos por lo tanto de racionalizar y modernizar nuestra arquitectura institucional de racionalizar modificar

y de garantizar la máxima igualdad posible tanto en la prestación de servicios como también en el pago de impuestos

piensa usted que es el momento apropiado para definitivamente proceder a una reforma de la ley de territorios históricos nosotros pensamos que sí en todo caso se lo pregunto y le pregunto sobre las medidas que va a tomar este gobierno para reformar el entramado institucional vasco

pero estoy dispuesto a dárselo permítame iniciar mi intervención

tenacidad y coherencia en el planteamiento de esta cuestión en la cámara por que efectivamente es así es cierto que intermitentemente es cierto que haciendo coincidir los momentos en los que plantea usted el debate con momentos también importantes y relevantes de la política vasca

la cuestión relativa a la reforma de la arquitectura institucional vasca y en concreto la reforma de la ley llamada de territorios históricos la ha planteado usted aquí de manera persistente y la ha planteado además creo que siempre de la misma manera creo que siempre

efectivamente usted ha hecho un pequeño recuento un pequeño repaso histórico de las iniciativas

en relación con este asunto yo he mirado un poco también los antecedentes y he visto constatado que hace

también en vísperas de unas elecciones municipales y forales como estamos ahora

instaba al gobierno a incorporar a su programa legislativo una reforma de la lth iniciada esta legislatura en el año dos mil trece también en el mes de enero presenta a la cámara una proposición no de ley

básicamente con el mismo contenido insta también al gobierno a que afronte a que aborde sin más demora

y le requiere a incorporar ese proyecto legislativo a su programa lo que pasa es que convendrá usted también que frente a su insistencia se ha encontrado también

que casi de modo reiterado y de modo mayoritario siempre le ha planteado la inconveniencia de su iniciativa

he repasado la interpelación la moción tuvieron lugar hace cuatro años en la pasada legislatura he visto lo que el gobierno anterior le respondió sobre el particular y he comprobado que en aquel momento le dijeron que usted quería comenzar

era imprescindible abordar una reflexión y hacer los estudios

y solo después de identificar los problemas abordar la reforma legislativa que en principio

en los albores de esta legislatura cuando en el mes de enero de año dos mil trece la mayoría de la cámara los tres grupos que usted ha citado en su intervención

los trabajos de la pasada legislatura no concluyeron es necesario que concluyan es pertinente y obligado por tanto retomar la iniciativa y la ponencia del grupo de trabajo

a efectos de que culmine la labor que se le encomendó por dos veces por tanto la cámara ha venido básicamente a decirle

es lógico que la cámara creo yo le respondiera en estos términos porque es verdad que usted ha sido insistente en el planteamiento

que nunca ha dicho exactamente qué es lo que hay que modificar y cómo hay que modificar usted siempre ha articulado su discurso con expresiones grandilocuentes

de modernizarla de actualizarla de suprimir duplicidades de limar ineficiencias bueno expresiones que están en la literatura

que quieren decir muchas cosas pero que pueden no llegar a decir nada si no se concreta exactamente en qué se traduce cada uno de esos principios cuando lo que se plantea es

porque fíjese su objetivo insistente es la reforma de la ley de territorios históricos pero curiosamente hoy mismo aquí cuando ha planteado los problemas que a su juicio

que teóricamente habrían de ser resueltos en primer lugar por la ley de territorios históricos nos ha hablado de la existencia de cuatro parlamentos de cuatro haciendas de doscientos cincuenta y uno municipios problemas que no dependen de la lth se reforme o no la lth los parlamentos serían los mismos

no incide sobre esas cuestiones por eso digo que como usted no decía nunca ha concretado qué hay que modificar y cómo hay que modificarlo

vamos ha hacer un análisis vamos a abrir una ponencia vamos a constituir un grupo de trabajo

que arranca del estatuto y que se desarrolla entre otras a través de la ley de territorios históricos y en función de los problemas que detectemos abordaremos las reformas si es necesario

que puedan contribuir a corregir esos errores o esas disfunciones y así fue el año dos mil once se creó un grupo de trabajo que elaboró

e impulsó comparecencias de muchos expertos ante la propia comisión pero lo cierto es que

concluir sus labores sin que alcanzara sus conclusiones por eso al principio de la legislatura usted pretende hacer tabla rasa

no concluyó su tarea y vuelve a plantear aquí la necesidad urgente de modificar la lth con lo que la cámara vuelve a decir lo mismo mayoritariamente no espere los trabajos de la ponencia no concluyeron vamos a

y vamos a volver a trabajar y vamos a concluir la tarea no concluida en la pasada legislatura y es así

la cámara mayoritariamente acuerda constituir una ponencia una ponencia que diseña sus trabajos que se constituye y que encomienda al gobierno la realización en principio de un informe que complete el que se elaboró por parte del ejecutivo en

y a partir de ahí se producen una serie de comparecencias el gobierno hizo lo que le encomendó la cámara primero elaboró

sobre análisis y funcionamiento del régimen institucional de la situación institucional en euskadi y después yo mismo inauguré los trabajos de la ponencia con una comparecencia en la que expliqué los contenidos del informe a partir de ahí hasta la información que yo tengo

en las que han tenido lugar diferentes comparecencias y hay hasta tres comparecientes que habiendo sido invitados a comparecer

la información de la que dispone este humilde consejero en relación con los trabajos de esta ponencia es que en este momento hay una propuesta de conclusiones ya elaborada y que los grupos parlamentarios han sido invitados a hacer sus aportaciones a presentar sus enmiendas a efectos de que

las conclusiones finales que arroje la ponencia como

sean lo más consensuadas posible incorporen el máximo de adhesiones posibles de la cámara por tanto en este momento no estamos ante el turno del gobierno

el turno no es del gobierno el turno es de los grupos parlamentarios que son los que en este momento han sido emplazados a hacer sus aportaciones para que las conclusiones de la ponencia sean lo más consensuadas posible el gobierno como hasta ahora por supuesto que está dispuesto a comparecer a contribuir a asesorar a todo aquello que le requiera la cámara pero yo creo que la cámara es suficiente por sí misma para debatir esta cuestión y para afrontar el reto que tiene en este momento y es el de

de conclusiones de la comisión o de la ponencia lo más consensuado posible en un régimen parlamentario cuando el parlamento aboca para sí o quiere reservarse para sí

el gobierno lo que hace es respetando la decisión del parlamento ponerse a su disposición y esto es lo que ha hecho el gobierno en este asunto por tanto ahora estamos en el turno de los grupos parlamentarios no en el turno del gobierno por supuesto que el gobierno reitera una vez más su voluntad

la cámara culmine su tarea y en la ponencia apruebe las conclusiones

se encomienda al gobierno la elaboración de un texto articulado el gobierno lo hará si la cámara prefiere consensuar internamente

pero el turno en este momento no es del gobierno es de los grupos parlamentarios la pelota está en la cámara porque la propia cámara lo ha querido así y lo ha decidido así el gobierno insisto hará lo que le encomiende la cámara a este respecto como ha hecho hasta ahora en relación con este asunto pero ahora en este momento el asunto está todavía en la ponencia

de duplicidades de la propia cámara porque así lo ha decidido la propia cámara eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

gracias presidenta efectivamente señor erkoreka tiene usted

y a la coherencia de upyd en relación a esta cuestión y también tiene usted

en relación a la necesidad de reformar la ley de territorios históricos esto es cierto de momento

la necesidad de reformar la ley de territorios históricos en todo caso esto puede cambiar y me da la sensación que las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios pueden haber evolucionada durante los últimos tiempos

en un breve plazo de tiempo quizás quince días haya ya una mayoría parlamentaria que efectivamente exija al actual gobierno tomar medidas concretas para racionalizar y modernizar el entramado institucional vasco y de paso presentar a esta cámara

de la ley de territorios históricos en cuyo caso usted me deberá reconocer que

ya en la cámara y pasaría a estar en la posición del gobierno vasco si efectivamente se produce veremos a ver nosotros vamos a presentar una moción para que este parlamento inste al gobierno vasco como en otras ocasiones lo hemos hecho a presentar

los grupos de la oposición a upyd en este caso siempre han dicho que no a esta propuesta de upyd y siempre han buscado digamos excusas es decir hay algunos partidos políticos que efectivamente no quieren reforma la ley de territorios históricos porque consideran

que no puede tocarse y que además no interesa abrir ese debate y luego hay otros grupos políticos que sobre todo en momentos electorales

a la hora de votar se posicionan en contra de upyd y todos sabemos a qué tipo

nos referimos nosotros vamos a seguir insistiendo para cambiar la posición de esos partidos políticos y para que esos partidos políticos definitivamente se mojen y lo que dicen

aquí yo creo que efectivamente ha pasado ya el tiempo de ponencias

es decir al menos en dos ocasiones se planteó como alternativa a la reforma de la ley de territorios históricos la creación de una ponencia

es evidente que era posponer la toma de decisiones posponer el debate es decir no creo que haya cambiado la posición de ningún partido político

muy sinceramente lo digo quiero decir que cada partido político mantiene más o menos

los técnicos en la materia políticos o determinados representantes institucionales sobre la cuestión

lo habremos tenido todos en cuenta pero ciertamente no creo que haya hecho variar las posiciones de los partidos políticos en todo caso yo le preguntaba al gobierno sobre cuál era su posición es decir nosotros no tenemos por qué presentar un proyecto alternativo o decir exactamente qué es lo que cambiaríamos no

si el gobierno considera que tiene que tomar algún tipo de medida para reformar el entramado institucional vasco a día de hoy y usted me dice que efectivamente no usted considera que no hay que reformar la ley de territorios históricos porque me imagino que tendrá opinión tendrá usted opinión una cosa es que la cámara

el gobierno tenga su propia opinión sobre lo que debería hacer ya digo para reformar la ley de territorios históricos y para modificar y modernizar

en unos días hay una mayoría parlamentaria que exige al gobierno la modificación de esta ley evidentemente los objetivos son claros clarificar las competencias reducir las duplicidades reducir los solapamientos que haya una mayor igualdad en la ciudadanía vasca eso son los objetivos que nosotros tenemos otra cosa son finales que defendería upyd que podría ser efectivamente la supresión de las diputaciones forales la supresión de las juntas generales o un proceso

lo urgente a día de hoy es al menos iniciar ese camino de reforma de la ley de territorios históricos usted dice que esto

en breves días ustedes se vean forzados por esta cámara para iniciar ese camino nosotros lo seguiremos intentando gracias eskerrik asko maneiro jauna